buenas tardes a todas y a todos cuando hay miles de ciudadanos estafados este parlamento no puede quedarse al margen no puede mirar para otro lado tiene que posicionarse

su opinión tiene que tratar de impulsar todas las medidas políticas que sean necesarias para proteger los derechos de los consumidores

lo cierto es que el pasado día veintiocho de febrero este parlamento se posicionó en contra de los estafados y tumbó una iniciativa de upyd que pretendía justamente lo contrario una iniciativa de upyd que pretendía defender a miles de ciudadanos estafados

y comercializadas por diferentes entidades financieras como sabemos a día de hoy

de duración perpetua y cuya liquidez más bien escasa o nula depende del mercado el problema fundamental es que toda la información de

sobre las características de este producto financiero no la tuvieron los consumidores estafados y ahí está el engaño masivo ahí está la estafa

el fraude los consumidores padecieron ausencia de información o información parcialmente contada o información tergiversada todo esto convierte a las aportaciones financieras subordinadas

y a su comercialización en una estafa masiva se trata por tanto de un producto legal pero comercializado de manera fraudulenta colocado a personas con las que existía un alto grado de confianza obviamente insisto ahí está la estafa ahí está el fraude ahí está

a favor de los consumidores engañados el problema es que haya habido entidades financieras que nos hayan transmitido a nosotros más información sobre este tipo de producto que a sus clientes una vez que el debate iba a ser traído a este parlamento ahí diferentes entidades financieras sí que tuvieron el interés de tratar de convencernos de las características de este producto y de contarnos que habían contado la verdad a los ciudadanos estafados

que esto es radicalmente falso el problema es que muchísimos de estos ciudadanos miles la mayoría de ellos ahorradores nunca inversores fueron

adecuadamente de que se encontraban ante un producto de alto riesgo con escasa o nula liquidez y perpetuo no sabían

según los testimonios con los que contamos fue a iniciativa obviamente de las entidades financieras que estos productos se colocaron inicialmente ni siquiera se conocían por lo que es impensable que se produjera una marea de solicitudes

por un producto que era desconocido fueron los clientes quienes fueron asesorados

de que este producto les interesaba y les convenía recibiendo como digo una información sesgada incompleta o manipulada una información insuficiente

ciudadanos que merecen y esperan una solución justa y estamos hablando en nuestra opinión de responsables que llevaron a cabo actuaciones muy poco honestas muy poco profesionales y muy engañosas que deberían ser localizados y castigados y a este fraude y engaño masivo se unen

directora de kontsumobide y afiliada del partido nacionalista vasco que se permite el lujo de olvidar cuál es su cometido tomar partido y defender a una de las partes por lo que la labor de mediación de kontsumobide queda automáticamente anulada la señora belén greaves en lugar de tratar de explicarnos dichas declaraciones

y convencernos de que puede seguir siendo directora de kontsumobide se niega a explicarse tuvo su oportunidad en la comisión y se negó a pedir perdón se

se negó a tratar de convencernos de que ella puede seguir siendo directora de kontsumobide obviamente no puede seguir siendo directora de kontsumobide la señora belén greaves sabía perfectamente lo que decía cuando fue entrevistada por un diario

sabía lo que quería decir quería sacar la cara tanto a los emisores

caja laboral de las aportaciones financieras subordinadas pretendió determinados intereses en lugar de defender los intereses de los ciudadanos estafados y esto obviamente es gravísimo y fueron opiniones coincidentes con lo que hemos escuchado también en este parlamento a portavoces del partido nacionalista vasco quienes obviamente pueden defender a quien quieran y como quieran

no es portavoz política del partido nacionalista vasco sino la directora del órgano encargado de la defensa de los consumidores por lo que es que se dedique a defender a los estafadores y a denigrar a los estafados en fin nosotros nos hemos reunido durante

y con personas afectadas por esta estafa hemos asistido y participado en charlas sobre la materia hemos preguntado oralmente al gobierno hemos interpelado al gobierno hemos solicitado comparecencias parlamentarias defendimos el pasado día veintiocho de febrero una iniciativa parlamentaria que no pudo salir adelante porque

volvimos a presentar una interpelación y hoy defendemos esta moción que consideramos sobre todo justa y absolutamente justa efectivamente hemos firmado una transaccional con el grupo socialista de varios puntos creo que es una enmienda muy

favorable de todos los parlamentarios de esta cámara en primer lugar queremos que este parlamento repruebe a la directora de kontsumobide la señora por las declaraciones en las que defiende la actuación de eroski y fagor al emitir aportaciones subordinadas y la de las entidades colocadoras al comercializarlas

que la función del instituto es la defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias por lo tanto proponemos que este parlamento repruebe a la señora belén

ni un segundo más como directora de kontsumobide querría destacar otro punto recogido en esa enmienda transaccional que para nosotros es

importante y que coincide lógicamente con lo que nosotros ya habíamos planteado en la correspondiente moción queremos que este parlamento inste

y a las entidades bancarias colocadoras a que adopten las medidas necesarias para que se proceda a reembolsar de forma inmediata

invertido por un lado a aquellos afectados y aceptadas con un perfil de riesgo conservador que así lo deseen

aquellos ciudadanos que no tienen experiencia inversora previa

formación suficiente estas personas fueron engañadas estas personas fueron engañadas y por lo tanto merecen que pidamos nosotros aquí el reembolso

invertido y también se reembolse a todos aquellos consumidores a quienes se les trasladó una información

tendenciosa incompleta o engañosa y requerimos a las empresas emisoras y entidades bancarias comercializadoras a que se reúnan con los afectados para encontrar una vía de solución en nuestra opinión estos dos puntos de la enmienda transaccional son los que nosotros consideramos absolutamente fundamentales para

de los intereses de los ciudadanos a favor de los intereses de ciudadanos que han sido estafados y que han sufrido un fraude y un engaño masivo

transaccional en fin termino porque efectivamente el asunto y lo hemos debatido en numerosas ocasiones y todos los parlamentarios saben perfectamente bien de qué es de lo que estamos este parlamento tiene que posicionarse a favor de los intereses de miles de ciudadanos que han sido engañados como dijo un estafado

en este mismo parlamento en la comisión correspondiente de momento este parlamento está de parte de los estafadores se trata de que este parlamento esté de parte de los estafados y por eso pedimos el apoyo al resto de grupos para que vote a favor

lehendakari quiero comenzar mi intervención recordando por qué estamos hoy aquí debatiendo de manera conjunta tres mociones

en torno al mismo tema señorías estamos hoy aquí para dar solución a un problema que afecta a miles de personas con nombres y apellidos y que la mayoría de este parlamento hace tres meses problema agravado con las declaraciones de la señora belén greaves en calidad de kontsumobide unas declaraciones en torno a las participaciones subordinadas de eroski y fagor negando cualquier responsabilidad de estas empresas y asumiendo que ni las empresas ni las entidades bancarias estaban obligadas las soluciones que se les pudiera proponer desde kontsumobide unas declaraciones muy poco apropiadas que deslegitiman a kontsumobide

digna a las subordinadas de fagor y eroski unas declaraciones que dieron pie a diversas reacciones y especialmente de las personas

que hace un mes este grupo parlamentario quiso obtener explicaciones interpelando al consejero de salud y consumo sobre las declaraciones de la directora de kontsumobide y lo único que conseguimos fue que el señor

se estaba haciendo bien y he de apuntar que el señor erkoreka portavoz del gobierno vasco decía hace unas semanas que la directora de kontsumobide había querido explicarse en esta cámara y que no había podido qué contradicción

ni siquiera se ha dignado a dar explicaciones pertinentes cuando ha tenido la oportunidad porque fuimos los socialistas quienes solicitamos

a fin de escuchar sus explicaciones y lo único que recibimos fue

y el desprecio más absoluto a este parlamento y a las personas afectadas

y a lo que demandan los afectados se limitó a levantar acta de las actuaciones de kontsumobide y no ofreció ni una sola solución al caso que nos ocupa

en otras partes y con otros casos se está resolviendo por pacto los socialistas vascos entendemos que se hace necesario fijar una posición

adecuada a los ciudadanos que han visto lesionados sus derechos como consumidores necesitamos una propuesta de actuaciones y responsables dispuestos

y hoy los socialistas vascos pretendemos reconducir esta situación es lo que nos han pedido los afectados que seamos valientes que seamos útiles que las instituciones y en concreto este parlamento demos una salida digna a su problema que hagamos valer sus derechos

decía el señor consejero de salud y consumo que con esta moción solo pretendíamos castigar a su gobierno curioso comentario quizás lo conciba para lavar su conciencia porque el grupo socialista trae a este parlamento

que trajo en el debate de febrero el grupo socialista trae a este pleno la misma voluntad de solución que plantean las personas afectadas

el grupo socialista trae a este parlamento la misma voluntad de solución que algunas entidades empujadas por la presión social están buscando con clientes con los que no han actuado de forma correcta y es curioso que sea el gobierno vasco que dice situar a los ciudadanos en el centro de la política

prefiere no enmendar el error y seguir dejando al borde del precipicio a las personas afectadas esto es situar al ciudadano en el centro de sus políticas digo alto y claro que no existen conspiraciones ni contra el pnv ni contra el gobierno vasco existe una mayoría

hay que hacerlas de forma diferente a como se están haciendo de hecho el partido nacionalista no ha tenido inconveniente hace unos días en reprobar a una concejal

está el pnv ejerciendo con ello un complot contra el gobierno minoritario del consistorio gasteiztarra o simplemente ejercen de oposición o acaso

de quién sea la persona reprobada hace unos días el gobierno vasco aprobaba en consejo de gobierno un extenso código ético y de conducta y es llamativo que esa responsabilidad ética no incluya la referida a atender los mandatos parlamentarios

que incluya medidas para evitar voces disonantes y no haya ninguna para cesar a quien simplemente no ejerce la función que se le ha encomendado en este caso la de defender los derechos de los consumidores y usuarios es legítimo

que respete lo que aquí hoy se decida para resolver el problema de las miles de personas afectadas por las participaciones subordinadas de eroski y fagor los socialistas esperamos que dejen de ver fantasmas conspiratorios

porque el pnv en otras instancias defiende los mismo que planteamos hoy los socialistas vascos en este parlamento

a que relean lo que el pnv dice en madrid en torno a las preferentes a la actitud de los bancos y a la actitud de las autoridades que lo consienten

no somos una isla por desgracia existen miles de personas

fundamentalmente pequeños ahorradores que están sufriendo una situación lo que no pueden sino considerarse como un abuso de confianza que a muchos de ellos una estafa pero parece que el pnv no quiere verlo o quiere mirar para otro lado porque cuando hablamos de preferentes hablamos de participaciones subordinadas

son incluso más complejas porque no es una sola relación de entidades bancarias y clientes sino de entidades emisoras comercializadoras y clientes señorías el fondo es el mismo

puedan pararse en figuras legales no es el problema que intentamos resolver aquí porque una ley contiene artículos de obligado cumplimiento y previsiones que no obligan se eligen podríamos poner todos los ejemplos que se nos ocurran

que una ley permita interrumpir un embarazo en unos plazos determinados no obliga a hacerlo y que la ley permita buscar fórmulas

no significa que haya que hacerlo aquí estamos ante un caso en las que unas empresas cuyos esfuerzos por salir adelante reconocemos expresamente han utilizado unas figuras legales y otras no lo han hecho estas empresas que han utilizado estas figuras las han comercializado a través de diversas entidades bancarias

han utilizado criterios de confianza por tres vías confianza del comercializador con el cliente confianza en que se ofrecía un producto sin riesgos

un producto de carácter perpetuo que no fue vendido como tal confianza en el nombre de unas empresas que transmiten a todos los ciudadanos

solidaridad competitividad y economía social esto es lo que ha pasado esto es lo que queremos solucionar hemos firmado un acuerdo transaccional con upyd que recoge cinco puntos básicos

en el primer punto pedimos la reprobación de la directora de kontsumobide belén greaves por las declaraciones en las que defiende la actuación de eroski y fagor al emitir

y la de las entidades colocadoras al comercializarlas sin tener en cuenta que la función del instituto es la defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias en el segundo punto pedimos que este parlamento

expreso a prácticas contractuales abusivas sobre todo cuando pretenden conseguir la confianza de los ciudadanos más vulnerables incluida la comercialización engañosa y fraudulenta de determinados productos financieros e instamos al gobierno vasco

erradicación en el tercer punto el parlamento vasco insta a las entidades emisoras y a las entidades bancarias colocadoras

con un perfil de riesgo conservador sin experiencia inversora previa sin cultura financiera y sin formación suficiente

a quienes se les trasladó una información insuficiente tendenciosa

recuperen el cien por ciento de su dinero y requerimos a las empresas emisoras y entidades bancarias comercializadoras a que se reúnan con los afectados

lo hacemos sabiendo las dificultades de las empresas emisoras lo hacemos reconociendo sus esfuerzos por mantener su actividad

porque si se busca una solución para quien la reclama reforzarán también la confianza de esas empresas en el cuarto punto instamos al gobierno vasco que establezca un servicio de atención a los afectados y afectadas por las participaciones preferentes

similares de entidades financieras y empresas donde se les facilite la información y los medios necesarios para poder ejercer cuantas actuaciones

precisas en demanda de sus derechos y si fuera necesario

a dichas actuaciones judiciales y en el quinto punto y muy importante instamos al gobierno vasco a que promueva la derogación del artículo ocho

de modificación de la ley de cooperativas de euskadi que es el origen de que miles de personas tengan sus ahorros atrapados sin poder aliviar sus economías familiares

solicitando responsabilidad a todos los grupos en un tema tan sensible y pidiendo que apoyen la propuesta transaccional pensando

miles de personas afectados con nombres y apellidos que evidentemente no voy a relacionar porque me llevaría todo el día por mi parte nada más

arratsalde on cuatro son los grandes puntos que desde eh bildu defendemos en la moción presentada primero la

segundo activar la acción del gobierno en el problema de las subordinadas dando soluciones tercero devolución del dinero a los y las afectadas y el cuarto

pocos han sido los casos en los que este parlamento ha cursado una reprobación contra algún miembro del gobierno o alguna directora o director

la reprobación es la última puerta que le queda en este caso a este parlamento

un problema que parecía encaminado tras la proposición no de ley aprobada por el parlamento

debería haber comenzado a encauzar y a solucionar los problemas que se le han generado a los y las afectadas por culpa de la venta irregular de productos financieros de alto riesgo es decir a las víctimas de la estafa de lo que públicamente se a venido a llamar las aportaciones subordinadas de eroski y fagor hoy aquí

y más concretamente en el departamento de salud y consumo la responsabilidad máxima

ha dado una lección pública de lo que no se debe hacer nunca en política su responsabilidad era alta quizá demasiado

o le ha venido o le ha vencido el orgullo y la prepotencia o ha sido una posible falta de preparación para el puesto que desempeña

un puesto el de directora que recordemos que no es de simple gestión palabra que desde el pnv se gusta mucho en utilizar sino que es un puesto que requiere empatía

y también altas dosis de crítica política a un modelo económico que no distingue entre personas y cosas y que se reserva los derechos del consumidor para el simple

una persona socialmente comprometida y no un gestor ni un administrador más esa es la gran diferencia

y se ha erigido como otro de los fiascos de este gobierno un fiasco muy importante ya que se ha demostrado la incapacidad de este gobierno y su falta de valentía para enfrentarse de manera directa y valiente al sector financiero y a sus desmanes desmanes que también se ejecutan desde las entidades financieras contra las arcas públicas vascas y que convierten a este gobierno y a todos los gobiernos en meros esclavos de un sistema financiero podrido por la avaricia y la corrupción

belén greaves tuvo varias oportunidades de poder resolver su desafortunada actuación

el resto de los grupos con desprecio nos negó la capacidad de preguntar

otra historia ni rectificó ni se disculpó con el colectivo de personas afectadas por la estafa volvió a no estar al nivel que su puesto le exige

de que aquí no hablamos de cifras no hablamos solo de dinero hablamos de situaciones personales de casos donde son las personas las que sufren por nuestras decisiones además de haber sido estafadas y arruinadas eh bilduk

ez du ondoriorik izango el señor erkoreka lo dejó claro la reprobación no tendrá consecuencias eso es lo que le gustaría pensar al señor erkoreka el gobierno empieza a estar tocado y tan solo llevamos unos meses de legislatura ustedes

un supuesto perfil mesiánico que les imposibilita errar

tanto en el pleno como en comisiones no creo que nadie aquí avale las bondades de estos productos financieros las dos cooperativas se pusieron en manos del banco

para crear un producto financiero con unas características muy particulares

en el menor tiempo posible no hace falta ser muy despierto para entender que la mejor manera de colocar estos productos era ofertándoselos a posibles clientes con perfiles de conocimiento bajo en finanzas utilizando para ello la confianza que los

domiciliaciones forzosas y venta de productos especulativos de carácter financiero de bajo nivel

los gobiernos ya habían de regularizado todo el sistema financiero y afrontaban la segunda burbuja de la década así introdujeron capital en el mercado de manera descontrolada

también para los que menos tenían o para los que solo tenían unos ahorros como entonces

y con ella se hizo visible la miseria tan grande en la que habían y han convertido el mundo y la economía los gobiernos vendidos al capital y en esa miseria nos encontramos

de la economía que no es otro que el financiero aquí nadie ha mencionado

yo lo voy a hacer porque también es bueno que la gente conozca la verdad de ese subnegocio que encontraron el banco santander y el bbva

y el negocio suculento pero menos rentable del resto de entidades financieras que pasaron a convertirse en entidades comercializadoras

simplemente como ejemplo en este caso entre eroski y el bbva y repito para que sirva simplemente como ejemplo en el contrato suscrito entre bbva y eroski figura lo siguiente y cito textualmente banco bilbao vizcaya argentaria sa ha participado en la presente emisión como entidad directora

de las aportaciones subordinadas eroski es decir no adoptó un papel secundario en esta trama sino que es un actor principal

dicho contrato sigue así como entidad directora única de la presenta emisión ha intervenido banco bilbao vizcaya argentaria sa y como entidad directora

que se cobrará únicamente en el caso de que el emisor es decir eroski complete la totalidad de la emisión es decir si se emiten finalmente las aportaciones financieras

asegurador a si el importe total de esas aportaciones colocadas

clientes externos durante el periodo de suscripción fuese inferior a cien millónes de euros a suscribir por cuenta propia

en la fecha de desembolso hasta un importe igual a la diferencia entre los cien millónes de euros y las aportaciones colocadas eso solo quiere decir una cosa

debería asumir la diferencia con los activos financieros del propio banco

estas subordinadas a las entidades comercializadoras o a sus propios clientes para no tener que comprar un producto a perpetuidad diseñado por ellos mismos por otro lado

un beneficio en relación a las ventas de las subordinadas diferenciando

y el resto de clientes recordemos que estas aportaciones tenían un valor nominal

euros cada una y el contrato dice así el emisor eroski abonará a las entidades colocadoras las siguientes comisiones de colocación y hablamos en millónes de euros

siempre que dichos trabajadores y socios presenten sus peticiones de suscripción como únicos titulares el cero coma cuarenta por ciento del importe adjudicado

clientes no socios la comisión variará en función del importe total de las peticiones de suscripción presentadas por cada entidad así

recibirían el cuatro coma nueve por ciento del importe adjudicado entre diez y veinte millónes de euros el tres coma cinco por ciento del importe adjudicado entre dos y diez millónes de euros el dos coma cinco del importe adjudicado inferior a dos millónes el cero coma cuatro del importe adjudicado esta repito es la emisión del dos mil siete de eroski a través del bbva

estos son los datos de las dos emisiones de las dos entidades que están pasando de momento de rositas y sus nombres son el bbva y el banco santander sin quitar ni un ápice de responsabilidad a las comercializadoras caixa banco popular caja laboral kutxabank etcétera a alguien le quedan dudas aún de los intereses que existían para la colocación alguien cree todavía que las entidades financieras no hicieron nada en este asunto visto lo visto contestará bbva y banco santander a la petición de comparecencia

muchas dudas se nos generan que necesitan de un posicionamiento claro por parte de este gobierno un posicionamiento favorable con las personas afectadas

y de ahí su reprobación argi daukagu

egin nahi dugu políticamente al gobierno solo le queda una posibilidad

escuchando al resto de los grupos políticos escuchando al colectivo de afectados y tomando la iniciativa para no causar más daño a las cooperativas y a sus trabajadores

a los que por la actuación de las entidades financieras hoy tienen secuestrados sus ahorros y sufren una situación que en ningún momento han buscado y que ha sido generada por la falta de control sobre el conjunto del sector financiero

sobre este problema y encaucemos las soluciones a nivel social

que hoy como poco debe ser reprobada eskerrik asko

han dicho que me ponga así más cerca porque soy pequeñito y no se me oye mahaiburu andrea lehendakari sailburuak

arratsalde on una conclusión interesante de una teoría

venía a decir que si por ejemplo una mariposa batía las alas en pekín se podría llegar a provocar un tornado en texas es la teoría del caos

en la que puede que por un minúsculo movimiento en un punto del planeta

este parlamento no es ajeno a ese encadenamiento de acontecimientos

y el congreso de la ugt en barakaldo eventos que aparecen como desconectados logran que un tercero más desconectado si cabe como una moción que está previsto

queda retrasada sin explicación alguna no una dos semanas es la primera vez que ocurre

hubiese sido bonito que hubiera sido consecuencia de la teoría del caos pero no es consecuencia de la teoría del trilero que va buscando el caos pero no el caos

no es el caos egoísta de desordenarlo todo para provecho propio

informados todos ustedes sobre la teoría del caos concluirán conmigo que el retraso de quince días en sustanciar estas mociones tiene que ver exclusivamente con la posibilidad de no haber ganado la votación del día veintitrés por la falta de dos parlamentarios o no conclusión

no les interesa otra cosa la solución para el conflicto origen de este nuevo conflicto tengo para mí no les interesa mucho no resulta sencillo elaborar un discurso

reiterar lo dicho por este parlamentario en nombre del grupo nacionalistas vascos hace solo tres meses el veintiocho de febrero yo sabía que hoy venía aquí a que me partieran la cara

de no querer solucionar un problema les invito a que lean

y verán si queremos solucionarlo o no en este período por cierto kontsumobide

recibir más de quinientos veinte reclamaciones ordenarlas analizarlas y reunirse un número importante de veces con las entidades emisoras y comercializadoras

para empezar a atisbar propuestas de solución al conflicto se puede pedir más en tres meses cuando alguien dirime un asunto que atañe a miles de ciudadanas y ciudadanos

pero esto no parece ser lo que hoy les trae con sus mociones porque básicamente les une la trísona bueno hoy cuadrísona reprobación a la directora de kontsumobide

en la reprobación no les preocupa apretar filas unidos pero cuidado es contra el gobierno ahí no hay problema de que upyd y pp se paseen del brazo de eh bildu al hilo de una entrevista en el periódico puesta la correspondiente megafonía de subjetivar

a la hora de espetar sus declaraciones a la directora de kontsumobide a pesar de sus

lo aquí dicho por el consejero de salud y la propia auto enmienda a la totalidad que efectuó la directora en comisión nada les ha valido pero confíese ni les hubiera valido su encadenamiento al puente de róntegui pidiendo disculpas su sentencia estaba dictada

no recalan en que está utilizando como coartada un conflicto real entre miles de ciudadanos quince entidades financieras y dos empresas de las más importantes de este país

están aprovechando el caso para debilitar al gobierno qué les importa el resto una vez unidos contra el gobierno juegan en sus mociones a intentar diversificar sus propuestas

upyd viene a decir lo mismo que en su propuesta del veintiocho de febrero pero elimina sutilmente

que lo había dicho en su día empieza fuerte y valiente

rembolsar de forma inmediata el cien por ciento pero enseguida sigue que se devuelva el cien por ciento pero solo a aquellos consumidores con un perfil de riesgo conservador que usted mismo define ya no se reembolsa el cien por ciento a los compradores solo a los que carecen de formación financiera y a los que se les engañó

lo cual nos parece justo usted sabe quiénes son esos inversores engañados o incultos financieros

o cree que los instados bancos de su propuesta deben ser los que diriman el conflicto

que es ni más ni menos lo que solicitamos hace tres meses nosotros conjuntamente con eh bildu

es que usted pide en el fondo lo mismo que pedimos nosotros y que usted tachó de estafa

aunque en esta moción no se atreve a señalar quién dirimirá su dilema si lo nuestro fue una estafa por proponer que dirima kontsumobide lo suyo de decir lo mismo pero sin proponer quien lo haga pues podría ser una propuesta trampa le suena el nombre el pse mantiene lo dicho

en este caso solicitan a las entidades financieras solo a las entidades financieras devolver el cien por ciento del capital invertido

pero por qué se debe devolver a todo aquel que ha invertido si una persona jurídica que las hay o alguien con conocimientos e información previa que las hay piden la devolución

las hay a sensu contrario en tanto el demandante demostradamente sabía lo que había hecho ahora transaccionan y ya están donde upyd y donde el resto pero de nuevo quien va a decidir los inversores de perfil de riesgo conservador si no un organismo público

es un brindis al sol otro sarcasmo y una estafa

aún sabiendo que es una propuesta injusta para al final de su moción a la chita callando solicitar al gobierno la mediación

de un pleno extraordinario de esta cámara respeto a eh bildu

siguen en la misma y vuelven a pedirle al gobierno de una manera genérica

algo que ustedes saben que no nos costaría nada afirmar es decir las tres mociones

vienen a decir con mayor o menor éxito semántico y con mayor o menor rigor lo mismo que el gobierno

y consumidores para encontrar el modo de que a los compradores sin formación les sea devuelto de una manera u otra la inversión realizada por directa indirecta o perifrástica

en resumen están de acuerdo todos con lo propuesto por el grupo nacionalistas vascos a pesar de lo cual no consiguen ponerse de acuerdo solo una transacción que suma uno a dieciséis

no acuerdan una solución para los ciudadanos pero sí votarán juntos una reprobación desde ayer hasta el pp porque en esto señor prieto en esto

lo del pp no tiene un pase ni enmiendan ni proponen ni nada a última hora

que solo se apuntan a la gamberrada cuando ya suman mayoría sin más no requieren más atención por mi parte que avisarles

están haciendo una política de gestos quizás no la más oportuna en el asunto que nos trae asunto en que los afectados solicitan soluciones a su problema y justicia concepto que requiere actuar equilibradamente para discernir en este caso entre tipos de consumidores en definitiva se está intentando sojuzgar a todo un gobierno en la cabeza de una directora

aprovechándose de las demandas de ciudadanos vascos sinceramente preocupados por sus inversiones reprobar solución al problema

la interesada lectura de una entrevista cuestiona la organización completa de kontsumobide cada uno con su motivo y todos contra kontsumobide

ante un conflicto de ciudadanos olvidarlo para crear otro conflicto contra el gobierno cuando lo que intentamos es hacer justicia

ustedes aprovechan para olvidándose de los afectados por la posible injusticia simbolizar crispación asunto que a los afectados por las subordinadas y a su cotización no les ayuda mucho

mostrar sus quejas háganlo es su democrática posibilidad pero no hagan demagogia de megavatios aprovechando las demandas de ciudadanos no hagan hipocresía diciendo que debilitar al gobierno es defender a los ciudadanos

cuestión que parece sencilla al hilo de una lectura sosegada de las diferentes mociones la demagogia y la hipocresía no son armas útiles ante conflictos ciudadanos en el fondo como dijo balmes la hipocresía más que engañar a otros engaña a uno mismo

muchas gracias señora presidenta señor tellería

volviendo al asunto que nos trae al pleno hoy que no es otro que el incumplimiento

hace varios meses que voy a recordar y la voy a leer textualmente la moción que el gobierno

pnv y bildu aprobaron que era que kontsumobide intervenga de oficio para resolver en los conflictos producidos entre los clientes que hayan adquirido activos financieros de riesgo y productos financieros similares

los nombres de lo que nos trae hoy aquí que son las aportaciones subordinadas de eroski y fagor porque ya desde ese momento

son empresas muy nacionalistas entonces había que tapar

de los bancos para bildu hoy la gran estafa es del bbv que por lo visto cobró según usted seiscientos mil euros y eroski trescientos millónes

y todos somos tontos todos somos tontos no claro

eso es lo que ha dicho usted aquí y eso es parte del discurso que tuvimos que aguantar hace ya unos meses y el que estamos aquí y señor tellería nosotros

porque era la misma solución que se aplicó en galicia el instituto de consumo gallego mediaba arbitraba entre los bancos

con las preferentes de los bancos gallegos y los bancos gallegos y nos parecía una buena solución

especificando para qué se hacía aquí y para qué se aprobaba eso aquí cosa que a los nacionalistas en su conjunto

qué ocurrió desde aquella fecha pues algo muy simple unas declaraciones de la directora de kontsumobide encargada de ser por este parlamento juez y árbitro entre y yo no voy a decir como decía el señor maneiro de que hay miles de estafados no lo sé ya lo dije la otra vez sé quiénes no son estafados

fueron los cooperativistas en sus asambleas los que fijaron los criterios y las condiciones de las emisiones

no nos vengan ahora aquí con cuentos de que los bancos o la gran banca mundial internacional tiene que devolver a quién a los que fijaron cómo eran las cosas

no necesitaban las entidades financieras hacer grandes cosas sí que había colas porque el ocho por ciento no daba nadie nada

y después del acuerdo en este parlamento vasco la directora que no hace más que seguir con la teoría nos dice que es que es evidente

y hay que investigar a las comercializadoras y uno dice bueno aquí estamos en la teoría esta por lo visto el bbv que tampoco es vasco el santander no es vasco pero el bbv tampoco es vasco entonces como los que son muy vascos son eroski y fagor esos lo han hecho muy bien

cientos de millónes de euros cada uno de ellos pero los malos son los que han cobrado la comisión

y en esas declaraciones ya igual que bildu que no sé por qué le reprueban si dice lo mismo que ustedes la directora de consumo dice no bbv y santander hay que analizar la comercialización

no sé porqué quiere censurarla si dice lo mismo que usted

no quieren que yo les arbitre si usted está de acuerdo con ella luego compareció

de todo lo que dijo que es que las entidades bancarias no crearon publicidad propia y mostraron los documentos legales de los emisores es decir de fagor

luego si fagor y eroski lo habían hecho muy bien y las comercializadoras la publicidad que tenían era la que les habían dado fagor y eroski pues o no había nadie engañado

nadie era responsable de nada todo se había hecho perfectamente por parte de todo el mundo en la comparecencia

y luego por supuesto ya tenemos el escrito a este parlamento del señor consejero diciéndonos que la directora ya ha explicado por qué no cabe el sistema arbitral claro

porque es voluntario porque las partes se tienen que someter ya lo sabemos todos y el

y todos los demás bancos gallegos el gobierno de galicia tiene la capacidad de a todos los bancos que operan en galicia

y el gobierno vasco aquí es incapaz de decirle a fagor y a mondragón que se sometan al arbitraje como no dependen para nada del presupuesto de este gobierno

varios meses después resulta que no puede arbitrar nada

qué han dicho fagor y eroski se les ha pedido que se sometan

porque eso era lo que habíamos acordado o lo que se suponía que se acordaba aquí hace meses

dos conclusiones una o desde el minuto uno cuando el gobierno y el partido nacionalista vasco trajo esta proposición de que kontsumobide resuelva esto

lo que estaba haciendo era quitarse un problemilla

engañando a todo el mundo a los afectados incluso a nosotros a los propios parlamentarios

o bien tenemos que reconocer otra cosa es decir no era un engaño sino que lo que hay es una incapacidad manifiesta y absoluta del gobierno vasco para el sustituto de consumo haga lo que se hace en otras comunidades autónomas

cuando son ustedes incapaces de decirle al grupo mondragón

con cuál de las dos versiones nos quedamos con que era un engaño desde el principio para tapar el tema o con la incapacidad del gobierno

nosotros discrepamos y mucho con el discurso que ha hecho el señor maneiro

hace tres meses no creemos ni que haya miles de estafados ni de engañados los cooperativistas ninguno

no es cierto que haya habido un engaño masivo habrá personas perjudicadas y que se les haya engañado y eso es

que no está haciendo y yo solo le tengo que decir al partido nacionalista vasco una cosa que se me está acabando el tiempo en esta primera intervención ustedes ven muchas pajas en el ojo ajeno

pero aquí hay que reconocer que son incapaces de ver no la viga sino el tejado entero que tienen ustedes en el ojo o sea su labor

ustedes están perjudicando con su actuación a las empresas y ustedes también

están haciendo muy flaco favor con lo que están haciendo ustedes

por negar la transparencia segundo por incumplir los acuerdos de este parlamento porque los que sacaron eran legales

todos porque para eso los aprobaron ellos lo que no tiene sentido es que vengan hoy echando la culpa a otros

de fagor y de eroski y no en ninguna otra ni en ningún banco está ahí y que si alguien tendría que devolver algo

a los que se les engañó que no sabemos si son muchos o pocos

que no y por eso nosotros no vamos a votar toda la enmienda que se ha presentado y señor tellería

señor tellería ya nos ha insultado suficientemente al resto de partidos políticos qué tiene que decir usted a los de ciudadanos afectados aunque sean decenas tiene usted

por esta estafa y por este fraude tiene usted algo que decirles o únicamente va a continuar insultando y menospreciando

y que se solidarizan con miles de ciudadanos afectados porque básicamente es lo que usted ha hecho ciertamente me ha parecido una intervención impresentable

de provecho propio de caos de venganza de cobardía de camorrismo de demagogia de hipocresía

diríjase por favor en su réplica a los ciudadanos estafados y dígales por favor algo deles usted

muestre usted su solidaridad con ellos lo están esperando lo están reclamando deje en paz al resto del arco parlamentario eso no es lo importante

a los ciudadanos afectados y tratar de plantearles una solución justa nosotros no queremos partir la cara a nadie como usted ha planteado ni queremos atacar al gobierno no al menos upyd en este asunto

queremos que se haga justicia y por cierto lo que ha habido aquí no es un conflicto no ha habido aquí un conflicto de intereses ha habido una estafa un engaño y un fraude y lo reitero miles de ciudadanos estafados eso es lo que ha habido aquí no ha habido un conflicto ha habido una

la pregunta por lo tanto que tienen que responder es esta ha habido o no habido una estafa según el señor damborenea parece que no ha habido una estafa

los tiene usted contabilizados nosotros pensamos que ha habido una estafa masiva una estafa generalizada un engaño generalizado un engaño masivo ha habido o no habido señores del grupo nacionalista vasco

no hay miles de ciudadanos estafados han hablado ustedes con ellos han visto sus caras han visto su preocupación han escuchado sus reivindicaciones

determinados intereses de determinadas empresas esta vez no sé si en solitario seguramente sí como hicieron el pasado día veintiocho de febrero qué es lo que van a hacer no estamos hablando de un producto financiero comercializado de manera fraudulenta no estamos hablando de esto

que no recibieron la información necesaria o que recibieron una información parcialmente contada o una información tergiversada miles de ciudadanos que recibieron una información sesgada incompleta o manipulada una información insuficiente tendenciosa

los derechos de esta gente esto es lo que tenemos que hacer nosotros en lugar de

de una determinada persona y de no decir más que barbaridades en relación al resto de grupos políticos yo no sé si había colas en las diferentes oficinas

que surge de ahí y que es vendido de manera fraudulenta y no se da la información completa y es por esto que efectivamente hay ciudadanos que quieren adquirir ese producto que no es otra cosa más que un producto tóxico un artefacto financiero esta es la realidad de los hechos lo cierto es que tras el debate y la votación del pasado día veintiocho de febrero uno se marchó con mal cuerpo

había dado la espalda a miles de ciudadanos yo mismo acuse a eh bildu y al partido nacionalista vasco de tratar de proteger los intereses

se corrijan y queremos que lo que aquí se apruebe se cumpla y en todo caso pedimos al gobierno pedimos al lehendakari que cese a la señora greaves y mañana preguntaremos por este asunto en el pleno de control proponemos

a quién señor telleria mismo planteamiento que el pasado día veintiocho de febrero a aquellos afectados y afectadas con un perfil de riesgo conservador que así

este tipo de producto no es para ofertar a personas con un perfil de riesgo conservador el simple hecho de hacerlo ya es una estafa

trasladó una información insuficiente tendenciosa incompleta o engañosa está usted de acuerdo con esto

usted defendería esto o no los miles de ciudadanos o aunque sean veintisiete que fueron estafados deben recibir íntegramente el capital invertido sí o no nosotros pensamos que sí y efectivamente a tal fin

kontsumobide no puede hacerlo y los estafados además no confían

y las entidades bancarias se reúnan con los afectados para encontrar una vía de solución esta es nuestra propuesta que ambos se reúnan y puedan encontrar una vía de solución justa esta es nuestra propuesta básicamente lo mismo que defendimos el pasado día veintiocho de febrero en fin yo en la última interpelación que planteé sobre este asunto hablé de tres estafas la estafa en la comercialización de estos productos tóxicos

la enmienda planteada entre el partido nacionalista vasco y eh bildu y la estafa que representa la señora

se añade en el debate de hoy una cuarta estafa

y la intervención del portavoz del grupo nacionalistas vascos gracias eskerrik asko maneiro jauna sarasua andreak dauka hitza jarraian

señor tellería usted ha bajado a esta tribuna intentando provocarnos

intentado llevar a todos los grupos a su terreno con los socialistas no lo va a conseguir

vamos a hacer lo que tenemos que hacer que es centrar a los ciudadanos en el centro de la política y vuelvo a repetir por qué estamos hoy aquí porque hay miles de personas con nombres y apellidos afectadas por las aportaciones subordinadas fagor y eroski que solicitan a este parlamento que hagamos valer sus derechos como consumidores y usuarios

y a los fraudes del mercado afectados señor tellería

por las declaraciones de un árbitro que se posicionó claramente por la otra parte y no voy a perder más tiempo comentando las palabras y la actitud de la señora greaves ni siquiera las suyas

incluso han presentado una enmienda a la totalidad a sí mismos y al actual gobierno vasco cada cual elige sus colaboradores como considera

y mira qué curioso tiene soluciones

el partido nacionalista vasco tiene soluciones para los españoles y no así para los vascos y para las vascas y a esto le llaman ustedes

al ciudadano en el centro de la política esto es lo que aparece en la página web de eaj pnv y esto es del veintiocho de mayo y voy a decir algunas cositas pedro azpiazu

dice la comercialización de las preferentes ha sido una auténtica estafa

las responsabilidades que les corresponda y las responsabilidades no están en manos de los afectados las responsabilidades están distribuidas

hasta la ventanilla habla de las preferentes lo más razonables es que todos los afectados recuperen el cien por ciento de su dinero

léase esto o escuche la intervención completa que yo la escuché anoche tres veces para que vea lo que digo yo es verdad

adquirido preferentes si se les hubiera explicado de qué se trataba lo dice el señor azpiazu

este político ha leído textos emitidos por la oficina del defensor del pueblo cuyo titular bueno no voy a seguir con la trascripción prefiero que ustedes se la lean por lo tanto señor tellería

con sus incoherencias de verdad porque hoy hoy hemos

mucho más que lo que ustedes han perdido que

a eh bildu le puedo decir que ojalá no hubiéramos perdido tres meses porque ustedes apoyaron una propuesta equivocada una transacción equivocada pero bueno entiendo que ustedes han venido aquí a denunciar una situación injusta

lo intentarán corregir pero no solamente hay que pedir la comparecencia del banco santander y del bbva los socialistas hemos pedido la comparecencia de eroski de fagor de caja laboral

porque para eso está este parlamento para escuchar a todo el mundo por supuesto los afectados ya les hemos escuchado por dos veces y si quieren volver aquí tienen su parlamento

porque este parlamento va a dar marcha atrás para corregir un mal acuerdo y ahora esperamos que el gobierno vasco cumpla el mandato del parlamento a rajatabla que se citen a las empresas emisoras a las entidades comercializadoras para que se sienten con los afectados

y que hagamos lo posible para evitar que nadie más en el futuro se vea envuelto en un problema similar reformando las leyes que sean necesarias

tenemos competencia para hacerlo y no basta con reclamarlo en madrid hay que hacer lo posible donde tenemos los instrumentos para hacerlo se llama autogobierno ejérzanlo porque los afectados en la actualidad parecen los más preocupados porque a nadie más le pase

y a esto tenemos que darle una respuesta en este parlamento y adelanto que los socialistas vamos a seguir en esta línea bueno

lo hace desde el mundo asociativo y pongo en valor en general el trabajo del movimiento asociativo y en particular la defensa de los derechos de consumidores y usuarios

y usuarios y por supuesto dar una salida digna al problema suscitado por la emisión de las subordinadas fagor y eroski y su comercialización por entidades bancarias

afectadas que vuelvo a repetir a día de hoy apenas tienen el cuarenta por ciento de los ahorros de toda su vida y no me voy a enrollar más simplemente voy a terminar reiterándome en mi petición sana y sensata solicitando

a todos los grupos responsabilidad en un tema tan sensible y pidiendo que apoyen la propuesta transaccional pensando y vuelvo a decir

son los ciudadanos y las ciudadanas vascas miles de personas afectadas con nombres y apellidos eskerrik asko sarasua andrea

contestarle al señor telleria que a mí también me gusta soy un gran seguidor de la teoría del caos

tres de los comportamientos que se han visto hoy aquí por un lado

en el siguiente pleno solo puedan ser tratados cuatro temas por un viaje en este caso la presidenta de esta cámara a una reunión de presidentes de cámaras autonómicas

por otro lado también explicaría como parece que hoy se está haciendo una reprobación al partido popular socio del bbva porque

al gobierno al que se le está haciendo esa reprobación lo cual también dice mucho de quien debe qué y para quién gobiernan unos representamos otros y la tercera

sería decir que la responsabilidad recae en euskal herria bildu de los tres meses de retraso que llevamos en el asunto de las aportaciones subordinadas de eroski y fagor teniendo en cuenta que

parte del gobierno en este caso del partido nacionalista vasco euskal herria bildu

incluso seguimos considerando que si no hubiese sido por la

kontsumobide hubiese sido una herramienta útil para la resolución de este problema yendo a la enmienda

y upyd decir que pedimos el voto por puntos les solicitamos el voto por puntos y que

o pedimos votar los cuatro primeros en un bloque y el último punto por separado

y por qué los podemos llegar a suscribir perfectamente desde el grupo de euskal herria bildu el primer punto reprueba a la directora de kontsumobide

en este caso en un medio de comunicación escrito el grupo euskal herria bildu solicitó la comparecencia inmediata

en la comisión de sanidad y consumo a su vez marcamos una hoja de no sé si de ruta pero sí que marcamos una hoja de qué debería hacer

de esta situación en la que nos encontramos ahora y de esta situación de bloque en definitiva

estaba escrita en nuestra propuesta desde el principio nosotros no hemos engañado a nadie está desde el principio lo proponíamos desde el principio

de no disculparse o retractarse de sus declaraciones pediríamos su inmediata dimisión y así lo hemos hecho hoy también en este pleno

el segundo de los puntos de lo que se habla es de la

de este tipo de producto financiero con el cual estamos totalmente de acuerdo incluso el partido nacionalista vasco así lo votó si no me equivoco en el primero de los puntos

en febrero en el tercer punto que parece que es incluso en el punto donde el señor damborenea tiene ciertas dudas la definición

en esta propuesta de transacción es la definición que se está dando a nivel judicial

es la definición que aparece a nivel judicial con lo cual

y que esas sentencias lo que están diciendo y están declarando es la nulidad de los contratos suscritos

comercializadoras y los afectados y afectadas o los estafados y estafadas

y esos son los términos en los que se está hablando a nivel judicial y donde se está poniendo la culpa a nivel judicial no se está poniendo ni en eroski ni en fagor

por la utilización de este tipo de productos pero más allá a nivel penal

en los contratos entre las entidades comercializadoras y los afectados y afectadas en el cuarto punto se habla de una cosa que nosotros proponíamos también en nuestra enmienda que es ejercer actuaciones judiciales precisas en la demanda de sus derechos

estamos totalmente y absolutamente de acuerdo y es que ya lo hemos repetido varias veces pero es labor de kontsumobide acompañar y asesorar a los y las afectadas por cualquier problema dentro del consumo en este caso hubiese sido

en principio no se debe articular absolutamente nada nuevo porque ese derecho ya

debería estar ya directamente articulado por parte de kontsumobide el quinto punto que es el punto que solicitamos votar aparte de la propuesta de transacción lo hacemos por una razón

a lo que se refiere con el tema de la financiación sino también con el concepto que tenemos de cooperativas

mire señor maneiro usted no es quien para decirme a mí que

seré el que diga a los afectados lo que pensamos aquí ya lo he dicho mil veces en comisión y en pleno

afectada aquí lo voy a decir el grupo nacionalista vasco

y que quiere buscar soluciones insisto me remito a las enmiendas que presentamos el veintiocho de febrero y hoy claro usted cree que eso no es ayudarles pero lo que no puede ser es que ayudarles a ellos sea

la enmienda transaccional que es la única fórmula de ayudarles no precisamente hay muchas y nosotros entendemos que la nuestra es la que puede ayudar

señora sarasua ha dicho que por culpa del árbitro se ha perdido la posibilidad de llegar a un acuerdo cómo lo puede decir usted que desde el primer momento no quisieron hablar de kontsumobide no lo citaron en ningún momento

en sus enmiendas a la pnl y usted dijo el otro día en comisión que desde el primer momento no querían saber nada kontsumobide es más una asociación de afectados

dijo desde el primer momento que no querían saber nada de kontsumobide si uno no quiere saber nada del árbitro y juega por su cuenta no puede echarle la culpa al árbitro de que el partido no funciona

eso es lo que ustedes han hecho en la transacción que han hecho con el señor maneiro han dicho que solo se le pague

perfil inversor eso es lo que dice la transaccional o sea

con lo cual no es al cien por ciento están ya matizándolo piden la reprobación de la directora de kontsumobide

upyd en su moción pedía que devuelvan el dinero a las entidades financieras

el partido socialista pedía que las entidades financieras devuelvan el dinero nada hablaban de los emisores eh bildu

siempre que en la resolución transaccional desapareciera los emisores

lo apoyó va a ser otra vez la teoría del caos

o va a ser la teoría de la relatividad es verdad según quién lo diga claro parece que después de oír las dudas sobre los emisores de la directora de kontsumobide en comisión también meten en su transacción a los emisores le reprueban

por cierto y vuelvo a insistir señora sarasua ese empeño en que no quieren para nada la intermediación de kontsumobide desde el principio

sí metieron una atención de kontsumobide a las subordinadas y también en el ayuntamiento de sestao pero si desde el principio no quieren que participe

la quieren para un asunto evidente de fraude al consumidor y nadie les ha reprobado por haber hecho un instituto que ustedes no creen en él

sabe usted señora sarasua quién gobernaba en españa cuando se aprobaron y visaron todas subordinadas y preferentes que hoy traen a tanta gente de cabeza ustedes fueron ustedes los que eligieron el gobernador del banco de españa y a los miembros de la cnmv

y nadie les ha reprobado apelo de nuevo un acercamiento a un consenso que pueda permitir abordar unánimemente una solución al conflicto

desde la unanimidad resultaría mucho más sencillo ayudar a nuestros conciudadanos

es que además más que debate político se ha acudido a la trampa a la trapacería y al engaño yo seré un faltón

no es hacer política decir en comisión que en una contestación del gobierno se le haya hurtado una información

y que no se lo habían entregado usted lo que había pedido era un documento con las líneas de actuación de asociaciones de afectados y lo que se entregó un mes después fue un sucedáneo de acta es lo que le interesa señora sarasua pues ya lo tiene

y eso no es verdad y nadie le ha reprobado por eso no es debate político acordar algo en la mesa de comisión y luego acudir al retorcimiento reglamentario para deshacer lo pactado

no es debate político decir que se retrasa una moción porque así se da tiempo al pacto entre los grupos

y nadie le ha reprobado usted señora sarasua y el resto de los grupos

de preso político en ningún momento salvo nuestro grupo llamó la atención al portavoz de una asociación de afectados cuando comparó las leyes aprobadas en esta sede con las que aprobó hitler y nadie les ha recordado

camino exento de aportaciones a la solución del conflicto se lo digo porque al resultar un engañoso discurso si lo obvia por su bien puede evitar que se cumpla aquello que dijo un alavés universal el riojano samaniego y se lo digo en pareado

porque ni siquiera se acepta el reconocimiento de declaraciones no del todo correctas ni siquiera que se reconozca un cierto error una autoenmienda a la totalidad la soberbia le ha llevado a buscar el mal ajeno dejando por el camino la honestidad de reconocer lo ya andado

donde hay soberbia allá habrá ignorancia mas donde hay humildad habrá sabiduría

y dicho esto que la paz sea con usted hasta luego eskerrik asko telleria jauna eta amaitzeko

muchas gracias señora presidenta señor

telleria yo sí digo y lo he dicho desde el principio y se lo repito ahora

por sectario y siento

no entiendo que bildu vaya a censurar por decir lo mismo que dice el señor de bildu

se han embolsado más de ochocientos millónes y los malos son el bbv y el santander

eso es lo que no termino de entender

nosotros le nombramos a este gobierno a este parlamento le dijo

que solucione eso eso es lo que le encargamos no soy yo el que va a decir si ha habido miles de estafados

y la actuación de este gobierno es que a día de hoy esa vía ya no sirve por lo que nos ha dicho el propio gobierno y por lo que ya conocemos todos

pues nadie acude a ese juez por lo tanto esa vía evidentemente está agotada

tellería me dice usted la venganza me lo ha dicho antes

usted sabe y su grupo sabe desde el minuto uno que esto iba a prosperar

no hubiera prosperado y usted lo sabe personalmente porque se lo dije yo y su grupo lo sabe porque se lo dije yo a ver a mí estas cosas no me gusta decirlas aquí pero si

cuando ustedes me preguntaron qué íbamos a hacer ya le dije lo que íbamos a hacer lo mismo que ustedes cuando no nos gusta la actuación de alguien se le censura

claro yo solo le quiero decir una cosa lamento

porque no solo opera aquí de estos afectados no solo hay vascos

que vascos afectados que han comprado esa deuda emitida

y eroski a la que ustedes califican de estafa a la que todo el mundo califica de estafa y nosotros creo que somos los únicos que hemos dicho que nos gustaría saber si hay una estafa y eso es lo que le encargamos al gobierno vasco

en fin que crean muchos puestos de trabajo y tienen muchos puestos de trabajo aquí y fuera de aquí

a todos los grupos pareceque se les debería de exigir una cierta responsabilidad empezando por el gobierno y lo peor que puede hacer el gobierno

es jugar a pensar que como son nacionalistas vamos a echar mierda

y vamos a tapar aquí y aquí no se ve nada y aquí no se soluciona nada

es lo peor que ha podido hacer este gobierno con esas dos empresas y con el grupo mondragón en esta actuación y ya para finalizar respecto a la enmienda transaccional

votaremos a favor de los dos primeros puntos en el tercero no ya sé qué es lo que dice la ley ya lo se

ya lo sé por eso primero sobra aquí y segundo se puede malinterpretar porque yo le he dicho hoy

que en fin que a mi no me puede venir ningún cooperativista que ha aprobado en su asamblea emitir estas obligaciones a decirme que es que le han engañado

me entiende por eso nosotros ya sé que esto es lo que dice él sí pero para los que lo dice

entonces por eso nosotros aquí nos vamos a abstener y evidentemente no vamos a apoyar

yo creo que a estas altura de la película huelga y sobra crear

otro no sé qué palabra usar no quiero usar la que me iba a salir evidentemente para no resolver nada y evidentemente si

pues no va a ser a través de otro instrumento u otro servicio público que se cree para lo mismo y

si ha habido un fraude si ha habido un fraude es porque se ha defraudado a la ley no porque la ley fomente el fraude y por lo tanto nosotros no vamos a votar a favor del último

gracias señora presidenta señor lehendakari

buenas tardes bien en dos mil catorce la emisora radio vitoria cumplirá ochenta años en las ondas alavesas realizando una labor importante informativa que forma parte ya de la historia de nuestro territorio histórico la historia de radio vitoria ha sido una historia pues también controvertida

compró a la caja de ahorros de vitoria la radio bueno el tiempo ha pasado radio vitoria hoy

tiene cabida en otros medios generalistas y en las últimas semanas la dirección de e i te be ha anunciado una serie de medidas que podrían desembocar no solo en una reducción de plantilla sino también en una importante disminución de programación

se corre y la opinión pública alavesa está mostrando su inquietud en este sentido porque teme que salga perjudicado un servicio público de calidad que ha sido siempre

de las enseñas de radio vitoria desde luego constituye un sin sentido objetivamente en un análisis

comience por una de sus referencias históricas más cercanas al ciudadano y menos sobredimensionadas y bueno en ese sentido pues nosotros presentamos

final hemos encontrado un fórmula de transacción también con otro grupo parlamentario con el grupo socialista la redimensión la reestructuración pública del ente

por radio vitoria pues lo que faltaba yo creo que las decisiones tomadas indican varias cosas en primer lugar

por torpeza por incapacidad no sé esperemos que no sea por malicia

para diluir a radio vitoria en radio euskadi para diluirla definitivamente

también vemos que puedan ser un paso hacia la desaparición definitiva de radio vitoria

la consecuencia y lo que yo creo es que indican una insensibilidad puesta de manifiesto muchas veces desde el nacionalismo hacia álava bueno hay varios hitos

de trasladar la dirección de la emisora alavesa a bilbao a los servicios centrales eso significa algo en relación con el debilitamiento de la estructura

la plantilla de radio vitoria pues nos llevan a pensar que el

comenzar una campaña de debilitamiento y de reducción de lo producido por nuestra emisora bien

todos sabemos todos conocemos qué es la radio si quiere además que sea cercana

en la radio personal las personas los profesionales es igual a horas de programación que periodistas y que trabajadores de una radio son sinónimo de

o de presentadores que personas y experiencia además son sinónimo de calidad informativa la televisión es muy distinta

películas se compran series documentales hay otro tipo de emisión hay otro tipo de información la radio es producción personal la radio es elaboración

de programas y de contenidos con actuaciones elaboradas por los propios trabajadores de la casa eso está claro eso lo conocemos todos y

de radio vitoria pues efectivamente así es es decir menos gente es el riesgo que se corre

significa menos programación propia es decir más conexión del cable en el enchufe de radio euskadi

bien desde mi grupo hemos analizado este tema desde luego con rigor y con exigencia miren además

no ha sido siempre terreno cómodo para el partido popular no lo ha sido nunca

muy crítico a veces en exceso y desde luego no lo hemos podido considerar nunca una radio

ni mucho menos pero lo hemos reconocido y la hemos reconocido y la reconocemos como una radio escuchada una radio cercana con información

emisora que ha trasladado noticias y contenidos que otras radios

no hubieran podido trasladas por sus obligaciones generalistas y por sus condicionamientos de horarios y de producción etcétera bueno radio vitoria sí lo ha podido hacer sí lo ha sabido hacer y en ese sentido nosotros se lo reconocemos y lo defendemos

en estos últimos años la unidad de negocio

ha hecho esfuerzos por hacer las cosas bien y eso también nosotros se lo reconocemos también

ha presentado en el ente público y esta radio corre el riesgo de pagar un precio por hacer las cosas bien y eso

e i te be se han firmado contratos mercantiles que no eran los más adecuados para las necesidades de personal y sin embargo radio vitoria ha buscado la idoneidad ha buscado la correcta contratación en las fórmulas jurídicas empleadas en la contratación no así

del ente público e i te be con determinados contratos mercantiles ciertamente irregulares además e i te be tiene cuatro canales

mantiene viento en popa sus delegaciones en pamplona y baiona es decir pensar

y mantener baiona mantener pamplona o reforzarlas incluso que seguramente irán por ahí los tiros eso no lo podemos entender tiene como

e i te be un diez por ciento de cargos de confianza que llevan en su puesto

y tiene un volumen muy alto de contrataciones desde luego en ese sentido y tampoco lo entendemos

en una interesante y amplia noticia en un medio de comunicación pues no

la torpeza o el desconocimiento como decía antes yo no quiero pensar en actitudes maliciosas ha marcado el punto de salida de la necesaria reorganización de e i te be por radio vitoria la entidad más saneada más dimensionada y más pequeña de las partes

tenemos que decir y eso es así que su éxito está contrastado radio vitoria

la única emisora de la red pública vasca que es líder de audiencia de seis de la mañana

datos objetivos es decir eventos deportivos eventos culturales acontecimientos festivos abundantes además en vitoria y en el territorio histórico de álava pues tienen un interesante reflejo

en las ondas alavesas además de radio vitoria tenemos que decir que la sociedad vitoriana alavesa está preocupada

y además está disgustada instituciones

personalidades de la vida cultural y social de vitoria de álava del país vasco han manifestado su rechazo a las medidas

y nosotros nos sumamos a estas voces también las hemos oído desde el propio partido nacionalista vasco por ello hemos presentado la siguiente

transado con el grupo socialista

considerado cinco puntos en la enmienda de transacción el primero de ellos lógico

de radio vitoria y sus profesionales a lo largo de las últimas décadas

en uno de los principales referentes de la información local de álava y vitoria y que forman parte de la propia historia de álava

el segundo punto es un punto directo contundente es decir que el parlamento vasco rechaza las medidas de reorganización de la emisora propuestas por la dirección de e i te be

de los contenidos de ámbito local son hasta cinco puntos el resto de puntos han sido los que forman parte del acuerdo

dirección de e i te be a que hasta que no concluya el plan estratégico cualquier iniciativa que se adopte

nos parece lógico y también el control parlamentario el parlamento vasco también

sean trasladados a los representantes de los trabajadores y se propicien medidas basadas en el acuerdo con los agentes sociales nos parece también algo

y al final también en una preocupación ya por el contexto general

trabajo de la prensa en toda la sociedad

reitera el reconocimiento expreso de la cámara a los profesionales de los medios de comunicación

entre las instituciones y la sociedad en este sentido muestra de nuevo su preocupación por la creciente precarización y deterioro de las condiciones laborales y profesionales del periodismo y deterioro que afecta a la calidad de la información y pone en riesgo el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz y plural efectivamente

el ente público vasco sino también el conjunto de entidades pero volvemos a decir radio vitoria es un ejemplo de funcionamiento radio vitoria es un ejemplo de cercanía con los ciudadanos funciona bien tiene buenos números y en ese sentido entendemos que hemos presentado una iniciativa
que no puede ser otra cosa que apoyada por la cámara muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

sí gracias presidenta quisiera empezar esta intervención reconociendo el importante papel que ha desempeñado radio vitoria

ocho últimas décadas radio vitoria efectivamente como aquí se ha planteado es para todos los alaveses una de sus

y para muchos de ellos incluso prácticamente la única es la emisora en la que han seguido la evolución de la política la cultura el deporte el entretenimiento

en la que se ha dado voz a colectivos de todos los colores y tendencias radio vitoria cumple desde hace muchos años una función de servicio público que ahora

tanto absurda como arbitraria de la dirección de e i te be que nosotros no compartimos y que rechazamos contundentemente

planteado una enmienda de totalidad en la que proponíamos que este parlamento rechace la propuesta de la dirección de e i te be de reducción de contratos en la emisora radio vitoria

ni de propuesta de reorganización ni de la citada emisora ni de la globalidad del grupo y porque como ha dicho el señor carmelo barrio ciertamente es extraño

del ente que nosotros sí reclamamos empiece por radio vitoria es ciertamente sorprendente y un grave error de la dirección general de e i te be por otro lado pedíamos instar

y a la dirección de e i te be a presentar en este parlamento en el plazo de tres meses decíamos un plan de redimensionamiento de reorganización ese tipo de plan que el grupo nacionalistas vascos siempre ha rechazado

reorganización y adecuación a las actuales circunstancias económicas de todo el grupo de empresas de la radio televisión pública vasca en dicho plan se contemplará una sensible reducción de los puestos directivos y de designación directa de la actual estructura y décimos que hasta que no se produzca esa presentación ante el parlamento

no procederá a realizar ninguna rescisión de contratos o despido de personal de la actual plantilla fija o temporal en las emisoras y canales del grupo esta era nuestra enmienda de totalidad por tanto esto es lo que nosotros pedimos que la nueva dirección de la radio televisión pública nos presente en el plazo de tres meses un estudio serio y riguroso de reorganización y redimensionamiento del grupo porque nosotros sí creemos que hay que adelgazar

reorganizar e i te be pero no precisamente radio vitoria una emisora que sí cumple con lo que nosotros consideramos que debe ser una radio pública de calidad y de servicio público en fin damos algunas ideas de por dónde puede recortar la dirección general de eitbren lugar de recortar en radio vitoria el centenar de cargos nombrados a dedo de jefes y jefecillos que controlan todo el grupo y que suponen el diez por ciento de la plantilla actual

en lugar de castigar injustamente y de manera absurda a radio vitoria este asunto lo vamos a debatir en breve en este parlamento porque hemos presentado una interpelación que se iba a defender mañana pero la consejera mañana no puede estar por lo tanto por ahí podría empezar

o que se ataque a radio vitoria cuando tenemos casi cien

jefes y jefecillos por lo tanto eso es lo que nosotros planteamos o alguna idea más algo que nosotros hemos venido reclamando en este parlamento durante los últimos cinco años el cierre de las delegaciones de pamplona y bayona el señor carmelo barrio también lo ha apuntado esas sedes de e i te be en navarra y en el sur de francia que no tienen otro objetivo que vendernos la idea de que vascos navarros y ciudadanos franceses del sur

en lugar de castigar radio vitoria o podrían también reestructurar todas las cadenas de televisión y hacer un estudio serio y riguroso sobre todos estos

nosotros pedíamos por lo tanto un plan serio y riguroso para racionalizar y redimensionar e i te be eso sí lo que no estamos de acuerdo y rechazamos de manera contundente es la pretensión de este nuevo gobierno de esta dirección general de e i te be de castigar injustamente absurdamente de manera arbitraria a radio vitoria

básicamente por falta de tiempo y porque no he podido comunicarme con los portavoces socialistas y popular ha sido un error mío en todo caso estamos de acuerdo básicamente en lo que aquí se propone y votaremos

legebiltzarkideok arratsalde on guztioi los socialistas vascos queremos reafirmar una vez más tres cuestiones básicas con respecto al derecho de información

la defensa del diálogo social la negociación con los representantes de los trabajadores de estos medios para hacer posible la eficiencia de ellos mismos y la defensa de que los medios tanto públicos como los privados desempeñan una función social que es la de hacer realidad el reflejo de la pluralidad de la sociedad y eso

tienen condiciones laborales dignas y un proyecto claro estos son los principios que venimos a defender en este debate surgido a nuestro entender

en torno a radio vitoria creemos que es errónea porque parte de un defecto de origen

antes de decidir los recursos somos concientes de las dificultades económicas por las que pasan

somos concientes de las que afectan especialmente a e i te be

de que hay que redefinir el ente y adaptarlo a la actual realidad económica y al contexto competitivo de los medios de comunicación y como somos concientes de todo ello fue este grupo el que planteó a esta cámara

pedir la elaboración de un plan estratégico para e i te be un plan que empiece definiendo el qué el modelo y adapte a ese contenido el cómo el cuándo y con quién

deben abarcar el todo y no ofrecer la idea de que están tomando soluciones parciales parcheos que

en criterios no sólidos cuando se nos dice que las medidas afectan a puestos eventuales que no son de estructura nosotros preguntamos es que no se está renovando ningún contrato eventual o temporal en e i te be la respuesta es que sí y entonces por qué

la conclusión a la que llegamos es que en este caso ha habido improvisación antes de explicar claramente

cuál va a ser su función y sus sinergias dentro del conjunto de e i te be se toman medidas

redundará en una merma del carácter y la calidad del servicio público la dirección del ente tuvo una oportunidad inmejorable para trasladar a esta cámara sus argumentos y sus intenciones

de e i te be pero no lo hizo y comunicó a los trabajadores que dejaba de contar con ellos tan solo ocho días después de la misma

a nuestro entender porque no hay un plan que la sustente por una parte

esto supone casi un veinticinco por ciento menos de plantilla con lo que difícilmente se podrá mantener la actividad y calidad de la misma pero también por otra se nos pretende tranquilizar diciendo que las medidas solo afectarán a tres o cuatro puestos

contratos temporales pero personas que sin embargo cuentan con una larga trayectoria en la emisora

cuál es entonces el problema desde nuestro punto de vista

entre otras cosas el plan estratégico está en fase de elaboración por lo tanto era difícil tener una idea de por dónde tienen que ir las cosas por eso

y no se está actuando sobre el fondo sobre la raíz sobre el tronco del problema sino que se están cortando ramas sin tener

de lo que se quiere hacer en última instancia bien en esta situación solicitamos que se reconduzca lo que se ha provocado con la decisión sobre radio vitoria

que se expliquen los objetivos y luego las medidas y que si estas afectan a puestos de trabajo se propicie el acuerdo con los representantes de los trabajadores queremos que se informe de forma conveniente al consejo de administración y a la comisión de control parlamentaria

y las medidas de adaptación que sean precisas estamos hablando de radio vitoria y quiero reivindicar

desde su concepción de servicio público quiero manifestar

que han hecho posible una andadura de ocho décadas y el arraigo de la emisora en la sociedad vitoriana y alavesa y también

al papel de todos los medios de comunicación tanto públicos como privados para hacer posible el derecho de la información desde criterios de veracidad y pluralismo para lo cual es necesario contar con profesionales que en sus condiciones puedan ejercer

este parlamento se ha pronunciado de manera unánime en varias ocasiones sobre esta cuestión

por el deterioro de las condiciones laborales de los profesionales de la información y sobre cómo esa precariedad afecta a la calidad de su trabajo lo hemos hecho ante determinadas actuaciones de diversas empresas privadas porque entendemos que los medios de comunicación aunque sean privados también desempeñan una función pública amparada por la constitución con más razón aún

se acaba por extender la sensación de inestabilidad laboral por eso pedimos que volvamos al principio a definir la radiotelevisión pública que vemos el servicio que debe prestar a los ciudadanos en el momento actual

debe llevarlo a delante es decir tenemos que ir

y no empezar cortando las ramas por otra parte como ya se ha comentado hemos firmado una

el respaldo de la mayoría de esta cámara con lo cual nos felicitamos

en mantenimiento valga la redundancia de la marca radio vitoria

y también el mantenimiento de la plantilla estructural de la plantilla que tiene radio vitoria en la actualidad yo no sé si todavía se siguen haciendo aquellas cosas castrenses y franquistas de las medallas al mérito pero si todavía continúan le propondría la señor barrio para la medalla al mérito a la valentía

un poquito de todo un poquito atrevido un poquito osado y un poquito valiente para venirnos hoy aquí protestando por la no renovación de cuatro contratos temporales y eventuales en radio vitoria cuando su partido está todos sabemos echando por miles a gente que vive de la información en otras comunidades autónomas y cuando digo por miles no lo digo

el pp gobierna en telemadrid gobierna en madrid mejor dicho y en telemadrid ustedes

con una chapuza de ere que luego fue recurrido y que tuvieron que dar marcha atrás en la comunidad valenciana en la radio televisión valenciana de mil doscientos noventa y cinco trabajadores se han quedado bueno han echado al setenta y cinco por ciento que son ochocientos cuarenta y tres personas es decir en total si las matemáticas no fallan

en diferentes entes autonómicos de información de radio televisión y vienen aquí a protestar porque radio vitoria no ha renovado seis contratos temporales y eventuales la diferencia son mil setecientos sesenta y dos personas señor barrio me parece

a defender esto sabiendo que le íbamos a recibir con estas cifras y las repito porque son muy fuertes

entonces eso qué quiere decir que ustedes donde gobiernan como ven que hay que aligerar

echan a esta cantidad de personas y donde no gobiernan aquí en lugar de entender o en lugar de apoyar o en lugar de ver que la medida de radio vitoria es solo de seis contratos eventuales temporales que no son seis luego se lo diré

se lo voy a repetir ya por última vez porque me parecen unas cifras que hay que escribirlas

radio televisión valenciana ochocientos cuarenta y tres personas el sesenta y cinco por ciento de la plantilla suma

que los gobiernos autonómicos del pp han echado en poco tiempo en las televisiones donde ellos gobernaban la justificación vamos con la justificación bueno primero voy a explicar

según la dirección de e i te be en radio vitoria no se han renovado seis contratos temporales eventuales y sin embargo también se ha dado de alta

el resultado neto son cuatro personas menos tres personas que acababan el contrato por fin de obra con lo cual tenía que acabar el contrato otras dos acababan el contrato por anulación de tareas

tenía que dejar la emisora es decir que no se ha echado a ninguna persona ni antigua

hay que no renovarlos no es echar gente es no renovar un contrato temporal y eventual y

cuatro personas en radio vitoria en su justificación de la pnl señor

hay que hacerla en tiempo pasado presente o presente continua usted puede decir que se ha hecho se hace o se está haciendo pero claro si usted tiene la bola de cristal y dice que podría desembocar

usted también dice en su justificación que la opinión pública alavesa está mostrando su inquietud

y también ha dicho que hay una preocupación grave en toda la sociedad alavesa yo ni entro ni salgo en eso

es el estudio general de medios el arma para la medición de radio más fiable

en los medios de comunicación el acumulado del dos mil doce la audiencia de radio vitoria

el once por ciento entonces cuando usted habla de que la opinión pública alavesa está preocupada puede que este preocupado ese once por ciento de oyentes el ochenta y nueve por ciento restante evidentemente no tiene por que preocuparse porque no escucha radio vitoria habitualmente

en oyentes en este momento en el dial de la provincia de álava entonces reiteramos lo que dice e i te be

continúa la programación local y también continúan el mantenimiento

también ha dicho usted alguna cosa de radio que no me parece que está muy bien yo señor barrio le reconozco que en muchas cosas me podrá dar lecciones pero es que yo he estado treinta años de mi vida dirigiendo

de la cadena de radio difusión privada más importante del estado y creo que de radio

que usted ha hablado de la plantilla de que el decremento de la plantilla incidía en la programación y no hay una relación directa se puede hacer una radio local muy buena

como para decir que porque haya cuatro contratos eventuales menos en radio vitoria se va a resentir la programación local en absoluto

querían diluirlo en radio euskadi en absoluto repito el compromiso de que va

y con su plantilla estructural también decía un algo del nacionalismo con álava también eso que también ha dicho la señora de bildu que entonces decía algo así como que radio euskadi es vizcaína

y que los pobres de álava nos quedamos sin ninguna radio hombre es que hay que saber que si

será más vizcaína que alavesa pero por pura proporción de oyentes habla más del athletic evidente es que sería lógico no hablará más del alavés yo creo que hay que situarse

tenemos en cada territorio histórico y luego por último voy a dejarle unas cifras también en contra de lo que usted ha dicho

ni juzgar ni decir si son buenas o malas pero creo que nos deberían de llevar a todos a la reflexión

la educación y las políticas sociales y evidentemente ahí hay que mantener como sea el gasto en la inversión pero puede que haya otros sectores más cubiertos por la

en los cuales haya que detraer algunos recursos le voy a dar tres cifras clarísimas que es la comparación entre los datos de la primera emisora

en nómina radio vitoria tiene cuarenta y ocho el triple esa emisora tiene cuarenta y cuatro mil oyentes radio vitoria tiene veinticinco mil casi el doble y esa emisora cerró el ejercicio del año doce

gracias señora presidenta señoras y señores parlamentarios me ha sorprendido

desagradablemente la intervención del señor ramírez escudero

tratando de justificar que hay que tomar medidas con radio vitoria y que poco más o menos

la inmensa mayoría de esta cámara y la inmensa mayoría de la sociedad alavesa está ahí es decir está bien ese planteamiento que ha hecho la dirección de e i te be que ya hemos visto y que ya ha sido juzgada desde aquí como un error cuando menos pero hay que hacer ese planteamiento y usted ha hablado

la de aquí la situación de aquí es perfectamente reconducible o sea que usted señor ramírez escudero vote la iniciativa que yo he presentado no sabía que usted está de acuerdo con lo que se ha hecho en madrid o en valencia

mire a mi me ha parecido que el partido nacionalista vasco esta mañana hablaba en el debate de garoña de ese partido nacionalista vasco económico

que sustentaba tanto tiempo garoña y nuclenor y el otro el de la pancarta el político eventual en los debates de cada

otro pnv señor ramírez escudero aquí hay otro pnv el pnv de aquí y el de allá y usted es del pnv de aquí a ver es que no hay más que ver es que no ha tenido ni siquiera

de traer como enmienda de totalidad de su grupo las iniciativas a las declaraciones institucionales

y en las juntas generales de álava por unanimidad con su voto en contra ni siquiera han venido aquí

a un acuerdo no no ustedes vuelven a ser reduccionistas en este tema y además

desagradablemente que la intención del partido nacionalista vasco es acabar con radio vitoria en un tiempo no no

señor uribe etxebarria es así yo creo que es así yo creo que

están empezando a dar los primeros pasos y a nosotros nos llama la atención por eso hemos traído esta iniciativa aquí para frenar ese riesgo que corremos para frenar ese riesgo que corremos y ya ha visto usted señor ramírez escudero

visto pues que en ese sentido en vitoria y en álava hay mucha preocupación

disgusto con esta circunstancia yo

nada más que decir yo creo que la cámara lo ha dicho los portavoces del resto de grupos a los que agradezco el apoyo a la iniciativa finalmente presentada han puesto de manifiesto una cosa independientemente de las valoraciones defensivas

de debilitar y de hacer mal las cosas en relación

tiene el riesgo que tiene y hay que explicarla de cualquier cosa en cualquier caso nosotros nos centramos en el hecho de que trabajadores

trabajadores en una radio es sinónimo de misión local elaborada

de programación propia y en ese sentido en la medida que se debilite que se reduzca que se despida a trabajadores que no se renueven

menos programación menos capacidad de hacer una radio cercana al ciudadano

y sin acritud además yo creo que es bueno que estas cosas pasen así que el partido que está en el gobierno en este caso y desde luego no el partido que está en el gobierno porque hay una dirección de e i te be reflexione sobre esta circunstancia todos los grupos parlamentarios salvo

el rechazo a la decisión de la dirección de e i te be y eso es algo importante que tiene que ser

azpimarratzearren en el consejo de administración pnv pse y pp votasteis en contra

de radio vitoria a propuesta de las y los representantes de euskal herria bildu el objetivo de la propuesta era que el consejo de administración de e i te be se posicionara en relación a los despidos de radio vitoria y por los votos contrarios de las fuerzas nombradas

real y claro de los diferentes grupos acorde con lo que hoy

la intervención de la señora breñas exige que haga una aclaración con respecto a la actitud que hubo en el consejo de administración efectivamente como usted dice

porque los representantes elegidos en este parlamento

del grupo eh bildu hicieron llegar la propuesta tarde y entonces había que incluirlo por mayoría

que se pudiera adoptar en aquel consejo de administración tenía que ser por unanimidad yo le voy a decir lo que dijimos algunos grupos entre ellos el nuestro y es que

el llegar a resoluciones porque evidentemente no se iba a llegar a que se aprobara ninguna en aquel consejo de administración esa fue la razón no

y además considerábamos que era de rigor hacerlo aquí en la cámara esa simple y llanamente la actitud que mantuvimos y esta es lo que hemos hecho en el consejo de administración insisto

teníamos que haber tomado la decisión por unanimidad y eso evidentemente

decía señor barrio que explicáramos nuestras medidas defensivas pero no tenemos ninguna porque nosotros estamos siempre al ataque y porque tenemos razones y sobre todo la verdad por delante y la verdad es que

de que alguien quiere acabar con radio vitoria y nadie ha dicho eso es más yo he repetido tres

el mensaje de la dirección de e i te be que es mantener la programación mantener la marca y mantener la plantilla estructural si después de escuchar eso cuatro veces usted sigue diciendo que alguien quiere acabar con radio vitoria

no tiene absolutamente ninguna por lo que veo nos ha acusado también de que teníamos que haber intentado negociar

con el grupo socialista y con bildu la diferencia está que ustedes se han enrocado en una frase en la que decían

no queríamos decir eso sino queríamos decir el mismo verbo de la declaración institucional que era que se pedía al ente público que reflexionara

y aquí ustedes dicen que rechazan nosotros no podemos rechazar eso ni

sin que desde el parlamento estemos rechazando medidas pequeñas de contratos eventuales cada día que las tomen y también

la moción de la enmienda de de que rechaza las medidas de reorganización es que no hay ninguna reorganización es que es como si en verano me imagino que en julio en radio vitoria entrarán en prácticas pues me imagino que seis siete ocho nueve las que sean

de la facultad de periodismo esa gente entra el uno de julio y acaba el treinta de septiembre

a diez personas de radio vitoria y será otra vez mentira como esto no es echar a nadie lo que pasa es que

entra en julio y acaba el treinta de septiembre evidentemente el treinta de septiembre se tiene que ir pero no se le está echando a nadie está cumpliendo su contrato de inicio y de fin

ha habido seis contratos temporales que se han

insisto el saldo neto son cuatro personas menos de contratos temporales en radio vitoria y le reitero lo que he dicho antes señor barrio hay que también

ponerle un poquito más de razón porque quizá pues cuatro millónes

y creo que sin que desaparezcan ni la estructura ni la programación local ni el personal pero hay que echarle un pensamiento a intentar racionalizar

de radio vitoria besterik ez eskerrik asko

banatuta bozkatzeko arazorik uno eta cinco aparte

bi en ese sentido pide que la justicia actúe con firmeza y celeridad ante todos los casos de violencia contra las mujeres

y llama a la ciudadanía y al conjunto de las instituciones y colectivos sociales a posicionarse

especialmente contra las mujeres denunciándola no consintiéndola no